sí muchas gracias presidenta con su permiso desde el escaño brevemente

la firma del acuerdo yo creo que es un acuerdo relevante los cuatro grupos parlamentarios salvo el grupo de bildu

fundamentado en declaraciones de organismos internacionales democráticos el parlamento europeo las declaraciones del secretario general de naciones unidas las organizaciones de defensa de los

objetivos que hemos podido apreciar y estudiar y analizar y desde luego con los que participamos y vuelvo a decir nos solidarizamos con la situación del pueblo venezolano

de maduro haciendo unas declaraciones el típico papelón que conocemos desde luego que cuando vemos a ese tipo de cargos hablando de las excelencias de un régimen que todos sabemos a mí

las detenciones de opositores las torturas la pobreza extrema el sometimiento judicial

los asesinatos las víctimas sin resarcir oídos

aniquilamiento de la libertad de expresión represión estudiantil es decir ese es el día de hoy

desmanes atrocidades injusticias de otro momento pues lo haremos no le quepa ninguna duda si hay vulneración de los derechos humanos lo haremos como lo hemos echo en cualquier momento

tienen un grave problema con los derechos humanos ustedes tienen un grave problema con los derechos humanos y usted ha venido aquí en expresión y en uso de la propaganda bolivariana al efecto pero desde luego usted señor lópez de munain no se ha comprometido

todos los días en venezuela y hemos hecho una referencia a todo lo que han sido pronunciamientos internacionales

en relación con esa cuestión recientemente vemos también que el presidente de la cámara legislativa

de importantes representantes públicos del ejército y de la vida política es decir eso es venezuela hoy eso es venezuela dictadura represión narcotráfico y empobrecimiento y efectivamente las desigualdades

se han reducido pero porque todos son muchísimo más pobres gracias a la actuación del régimen de chávez y de maduro muchas gracias

usted ha mencionado a la derecha golpista en su enmienda a la totalidad menciona

al gobierno de españa a las multinacionales o transnacionales e insta a que se deje de financiar a los grupos que lideran el golpe de estado blando creado contra la voluntad expresada democráticamente en las urnas con la mayoría de la ciudadanía yo soy el primero en denunciar los golpes de estado todos

los dos golpes del setenta y tres en uruguay y en chile setenta y seis en argentina sesenta y ocho en perú

contra el presidente maduro condeno

en la política los atajos no valen no valen

el teniente coronel de paracaidistas hugo chávez frías dio un golpe de estado contra el presidente carlos andrés pérez

socialista legítimamente elegido por el pueblo venezolano teniente coronel mes de febrero golpista en fin a lo mejor les suena de algo y en ese golpe de estado murió mucha gente entre

hijo de domeka etxearte histórico militante nacionalista vasco

que también se tuvo que exiliar con sus padres a venezuela porque aquí un cuarterón de generales el dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis

de ingeniería de alcanzó una bala de los golpistas y murió en los brazos de su aita por lo tanto aquí no vamos a hablar de golpes de estado porque quien

no es alguien que crea en la democracia ni que sea demócrata

yo creo que todos los golpes de estado tienen la misma intencionalidad es querer imponer por la fuerza un modelo

lógicamente bajo las armas y el que utiliza las armas

de esos hemos visto mucho en américa latina y aquí eta nire ustez estatu kolpe bat ematea

señor lópez de munain de verdad que si maduro tendría que elegir un defensor

porque lo primero que hay que hacer para defender una causa es hacer autocrítica análisis de la situación no negar que existen los problemas

no hay problema económico no hay problema de libertades no hay problema de violencia

defender un problema es evitarlo cerrar los ojos taparse los oídos y hablar solamente con demagogia es decir halagando a quien quiere ser halagado a quien quiere usted halagar lo único que ha hecho usted es halagar tiene que corregir porque la situación de venezuela como de cualquier otro país no se soluciona si no se reconoce al opositor si no se reconoce al contrario y usted lo que ha hecho es eso

de golpismo que por cierto antonio ledezma todavía hoy no tiene más acusaciones que las que le han hecho desde el gobierno no hay ninguna prueba

su proceso está paralizado por eso precisamente porque no hay acusaciones no hay pruebas de que él intervino en ningún de actuación ilícita sino que ha habido las acusaciones del gobierno y eso ha hecho que una persona elegida democráticamente tan democráticamente como maduro estoy en la cárcel sin ninguna prueba más que las acusaciones del gobierno e insisto tan democráticamente elegido el señor ledezma como el señor maduro por lo tanto

y veo que usted señor lópez de munain no va a entrar en eso es el diálogo es la apertura es que las elecciones que vienen en este año

para qué para que los venezolanos y venezolanas puedan vivir mejor que es lo que a nosotros a los socialistas

eh bildu en relación a esta cuestión en fin no solamente ha negado

y ha defendido la vulneración sistemática de los derechos humanos en aquel país consecuencia de lo cual miles de venezolanos están sufriendo represión todos los días del año

por lo tanto este es un tema muy serio y ustedes en fin cuando planteamos estos problemas que son absolutamente ciertos y que están perfectamente demostrados por estudios independientes por los países democráticos y por las personas

ciertamente en fin la enmienda de eh bildu como su discurso

lamentable que provocaría risa si no fuera cierto y no estuviera perfectamente demostrado que en venezuela no hay libertad de expresión se vulneran derechos humanos básicos

a los opositores políticos está implantada la censura y la situación de pobreza

y esto evidentemente no puede ser respetado sino contundentemente denunciado se pueden denunciar muchos regímenes de otros países que a día de hoy

en fin de todo eso podríamos debatir también largo y tendido pero el asunto de hoy es observar cuál es la situación en la que se encuentra y venezuela a día de hoy es una dictadura por lo tanto ya digo en fin son datos ciertos y comprobados por países democráticos e informes absolutamente

usted justifica todo ello justifica las detenciones sin garantías judiciales la existencia de cárceles convertidas en tumbas las torturas y los malos tratos la censura la corrupción usted censura todo esto todo esto a usted le hace gracia

por haber planteado esa enmienda que incluso compañeros de su propio grupo tendrían que haberle dicho a usted o a quien corresponda que esto es absolutamente indefendible y que es ciertamente

una enmienda semejante que insulta a la inteligencia y que insulta a miles de ciudadanos venezolanos yo en fin a mi amiga venezolana le mandé la enmienda de eh bildu

expusiera con la claridad que les caracteriza su opinión sobre la cuestión y mi amiga venezolana se la transmitió a un amigo suyo venezolano y la respuesta

y dentro de la mierda esta es una falacia argumentativa que continua respetando todos los acuerdos internacionales dice no no respetan los acuerdos internacionales

una persona que está sufriendo todos los días una cruel dictadura se ha traído este asunto a este parlamento y evidentemente nosotros no hemos podido querer no hemos querido mirar para otro lado sino evidentemente solidarizarnos con miles de venezolanos que sufren esa situación

lo menos que se puede hacer es apoyar esa transaccional eskerrik asko maneiro jauna

o que estaban hablando ustedes sobre el estado español cuando hablaban de

torturas el problema es que se han encendido bastante más cuando eso dicen que sucede fuera que cuando sucede en sus propias casas esa es la gran falacia

que acontece en el parlamento europeo ese parlamento en que en

llevadas por el partido popular europeo para desacreditar el gobierno legítimo de venezuela

como una democracia porque tanto unos como otros al final entran a desacreditar sus propias argumentaciones

como puede serlo maduro están encarcelados o pueden ser encarcelados otros niegan la capacidad incluso niegan que exista una democracia en venezuela

lo que se alinean es con la línea con la geoestrategia de estados unidos las empresas transnacionales y vuelven la de siempre vuelven a girar su política en relación al poderoso y no en relación a la justicia de los pueblos y al respeto de la soberanía de los pueblos en sudamérica

a la cámara ha tenido esas dos iniciativas y una de ellas es venezuela me gustaría saber si venezuela es realmente un problema para este gobierno

de las dos únicas iniciativas que ha traído el grupo mayoritario de esta cámara para que sea una de ellas venezuela esto es lo que marca la línea

internacional del gobierno vasco el apoyo a los golpistas de la derecha venezolana

la decisión soberana de un pueblo esa es la nueva política

ustedes del pnv que exigen respeto para la soberanía de este país ustedes deberían tener el mismo respeto a la soberanía

que si hay carencias no hay carencias y yo lo he dicho y lo he dicho desde el principio de mi intervención primera he hablado que existen problemas y muchos de ellos muy graves en venezuela

ustedes siempre las sitúan en el mismo sitio y nunca responsabilizan de absolutamente nada aquellos que causan toda una desestabilización

en toda la región de sudamérica ustedes son acríticos con aquellos que tienen el poder ustedes critican a aquellos que nacionalizaron las empresas energéticas

ustedes responsabilizan a aquellos que tienden o que por lo menos aplican una política contra los medios de desinformación muchos de ellos que son propiedad de medios del estado español asentados en venezuela como ocurre en argentina

ustedes siguen desinformando ustedes han hecho ustedes y sus grupos europeos que europa no pinte absolutamente nada en política internacional y no pinta absolutamente nada porque europa no deja de ser el monaguillo de estados unidos

hoy sí que volvamos a hacer que en este pleno y recordarán cuando traje el tema de grecia y me hablaban ustedes de que era una pérdida de tiempo cómo podíamos traer un tema de la soberanía de otro país a debatir en este parlamento ustedes sí lo pueden hacer ustedes claro que lo pueden hacer pero en esa europa que tanto preocupan los derechos humanos de venezuela no les preocupan en absoluto los derechos humanos en grecia

se posicionan con los golpistas en ucrania no les preocupa que

no creo que sea para poner una democracia según su teoría a mí me gustaría recordartambién a aquellos

militar en el internacionalismo vasco están siendo juzgados y han sido juzgados por la audiencia nacional

que ustedes demandan para venezuela no la tienen para la audiencia nacional

en el internacionalismo porque ni ha sido ni es ni será delito el internacionalista no es delito como se dice en venezuela

foronda no porque lo hayamos traído en otras ocasiones sino porque otros grupos han sido los que en otras ocasiones han planteado este asunto que pensamos que sigue de plena actualidad puesto que este aeropuerto pues sigue sin despegar sigue sin usarse como merece y sigue sin

mejorar su situación a todos los niveles lo cierto es que un informe encargado por el gobierno vasco concluía recientemente que el

de vitoria constituye la mejor infraestructura aeroportuaria de euskadi por delante de loiu bilbao y hondarribi san sebastián por ser la más amplia la más segura

la pista de foronda es sin lugar a dudas

de la comunidad autónoma para albergar vuelos intercontinentales y vuelos en general foronda sin embargo lleva años sin apenas vuelos regulares de pasajeros hace dos años vio como aena reducía su plantilla y horario y como durante los últimos tiempos desde las diferentes instituciones no se ha hecho lo que se debía hacer para mejorar la situación aeropuerto justo ha sido lo contrario reducción del horario

y falta de apoyo institucional más allá de las palabras

sino que políticamente se benefició

como el de zaragoza por simples intereses electorales o partidistas sin justificación racional que pudiera ser defendida y argumentada

los gestores de los aeropuertos españoles han hecho una nefasta gestión en los últimos años y que las instituciones no han actuado correctamente en relación a foronda

muchas palabras pero a la hora de la verdad absolutamente nada foronda es el mejor aeropuerto vasco y seguramente el mejor aeropuerto del norte de españa y cómo es posible que no haya habido voluntad política para darle el uso que puede dar y que la ciudadanía necesita por qué no ha habido voluntad política para apoyar a foronda una infraestructura

infraestructura que está muy bien y que como digo es la mejor de euskadi es más por qué ha habido una evidente voluntad política de perjudicar a foronda curiosamente el aeropuerto con mejores condiciones para atender a las aeronaves en la comunidad autónoma vasca es el único que apenas dispone de vuelos

para el aterrizaje y sobre todo el despegue de todo tipo de aeronaves puede operar incluso la mayor aeronave comercial de la actualidad el airbus

pasajeros pero la compañía low cost irlandesa voló iberia también lo hizo

en dos mil trece todos de vuelos charter u operaciones especiales no hay vuelos en foronda porque no hay servicios y no hay servicios porque no hay vuelos

en agosto de dos mil doce de veinticuatro horas a doce horas y por la noche y no salimos de la situación en la que nos encontramos lo que realmente urge en vitoria es mantener la actual actividad carguera

y además diversificarla porque depende demasiado de apenas una o dos compañías

foronda es menos atractivo y en relación al punto de inspección fronteriza el propio informe señala que es una instalación estratégica y vital para

o animales vivos el aeropuerto de foronda tiene una pista adecuada como digo para vuelos internacionales

con muchos menos problemas que loiu en materia de seguridad a poco más de media hora de bilbao y a una hora de san sebastián por carretera estos tiempos son similares o incluso menores a los que se tienen que soportar para acudir

internacionales en fin el aeropuerto de foronda puede cumplir en nuestra opinión perfectamente las funciones de aeropuerto regional para vuelos de larga distancia internacionales de referencia para la comunidad autónoma vasca y también para comunidades vecinas únicamente lo que se pretende y lo que pedimos nosotros es que haya voluntad y que se tomen las decisiones adecuadas para que efectivamente esto sea posible y creo que todos los grupos sin excepción en este parlamento sabemos perfectamente cuáles son esas decisiones que deberían tomarse de hecho algunas de ellas están también recogidas en la enmienda

el grupo socialista y el grupo nacionalista vasco las hemos debatido en innumerables ocasiones en este parlamento

el hache veinticuatro es decir que esté abierto las veinticuatro horas del día los trescientos sesenta y cinco días del año para acoger vuelos es imprescindible recuperar el puesto de inspección fronterizo que permite la entrada de productos perecederos y animales vivos uno de los nichos importantes de negocio de la carga de foronda es necesario recuperar el proyecto industrial que se proyectó en su momento durante la legislatura anterior

con la aeronáutica y otras hay que impulsar foronda como el aeropuerto de referencia del norte de españa para vuelos internacionales

de la península ibérica en fin el informe encargado por el gobierno vasco coincide con esta apreciación

vuelos intercontinentales y acoger las aeronaves más grandes que operan en este momento en fin la sociedad via también tiene mucho que decir y hacer la sociedad que promociona de foronda y hacer todo lo posible para efectivamente traer vuelos vuelos y más vuelos para que foronda que es una infraestructura que está ya construida y que está muy bien vuelva a ser útil al conjunto de los ciudadanos vascos

esto es lo que reclamamos evidentemente ya digo que muchos de las medidas que deberían tomarse las compartimos todos yo he leído intervenciones suyas en otros debates y todos décimos cosas

sabemos las cosas que se han hecho mal por parte de los diferentes gobiernos y sabemos lo que debería hacerse en fin yo les propuse a los diferentes grupos una enmienda

todas esas medidas pero finalmente se rechazó porque no se incluía en esa transaccional lo que sí se incluye en la suya que es la famosa

yo no creo en absoluto que la transferencia vaya a beneficiar a foronda no lo creo no creo que sea el asunto

otra serie de medidas ya digo que estaban recogidas en esa enmienda de transacción que les propuse

están recogidas en la enmienda de transacción que ustedes han firmado

en votar a favor del primero de los puntos se han votado en este parlamento muchas cosas en relación a esta cuestión se han dicho muchas cosas

el tiempo pasa y nada se cumple creo que habría que pasar de las palabras a los hechos espero que este debate sirva al menos para ello y sirva también

los diferentes grupos algunos de ellos muchos de ellos coincidimos fundamentalmente en qué es lo que debería hacerse para que foronda efectivamente

los ciudadanos vascos nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna

presidenta señorías quizás lo que puede llamar la atención sobre esta iniciativa

es que son tanto esta iniciativa como la que ha retirado el partido popular

aproximadamente hace un año es decir que ha habido tiempo incluso para que estas iniciativas las dos se hubieran podido retirar

algo de lo que se viene planteando desde hace muchísimo tiempo

en septiembre se comunicó que se cancelaba

por falta de pasajeros es decir que una de las

apuestas que tiene la voluntad política mayoritaria de esta cámara que son determinado tipo de vuelos pues

una importante inversión se hizo un acuerdo interinstitucional y se pretendió hacer algo muy puntual que yo creo que como ya tuve oportunidad de criticarlo en su momento no tenía demasiados sentido porque cada vez que hay alguna razón para moverse un poquito pues que llegan una selecciones o que hay demasiada presión mediática o lo que fuere

un vuelo a mallorca un vuelo

muy puntuales pero siempre sin un plan sin una idea clara

que tenga continuidad en el tiempo porque el problema o lo que hay que destacar en relación con foronda

aquí de las virtudes se ha reiterado de la calidad del aeropuerto en fin con el tiempo probablemente las virtudes irán a menos porque se hará viejo el aeropuerto

no se terminan de hacer las inversiones que desde el año dos mil once están comprometidas porque no quiere el gobierno actual de españa no quiere hacer esas obras de apoyo para dar más servicio a lo que significa este aeropuerto y a las

este aeropuerto y por lo tanto con el tiempo hasta estas virtudes probablemente si sigue así irán decayendo entonces yo creo que lo destacable del aeropuerto de foronda como digo no son

lo destacable del aeropuerto de foronda es que hay un gobierno del partido popular mayoría absoluta en españa al que le quedan supongo espero

no quiere darle a este aeropuerto en función de su capacidad

posibilidad de dar ese servicio logístico no quiere darle el papel y el protagonismo que se merece y que ya tenía antes de llegar a ser gobierno por mayoría absoluta este es el gran problema supongo que por eso también el partido popular ha retirado su iniciativa porque hoy

indefendible cualquier posición del partido popular en relación a foronda porque lo único que cabe esperar de

absoluta es que si realmente quiere hacer algo por el aeropuerto de foronda lo haga que avance en el

que avance en cualquiera de los servicios que se ha ido cargando y que mes tras mes año tras año no ha repuesto se dijo

que no había ningún problema con foronda que cada vez que se necesitara estaría abierto se planteó que era insostenible el aeropuerto de foronda anterior porque generaba unos costes tremendos hace muy poco lo volvió a reiterar el gobierno

clara estrategia de ir potenciando o de haber ido potenciando aeropuertos de nuestros alrededores y haber ido dejando morir el aeropuerto de foronda esto ha pasado con el de zaragoza ha pasado con el de burgos

la estrategia del gobierno de españa ya decidida hace mucho tiempo fue la de cargarse foronda fue la de reducir su plantilla a unas expresiones mínimas en más de cinco veces ha reducido esa plantilla en cargarse todos los servicios en cargarse todos los vuelos de pasajeros

este es el cuadro esta es la realidad yo creo que aunque sea reiterativo el haber traído esto hoy aquí me parece bien que se haya traído porque el problema sigue pendiente

otra vez por una mayoría amplía con esa enmienda transaccional que hemos hecho se pueda posicionar reivindicando el papel que tiene que jugar este aeropuerto y apostando por una estrategia aeroportuaria tanto para euskadi como para españa como internacional totalmente diferente pero yo creo que este es un compromiso que hoy lo vamos a renovar pero más con la y con la expectativa puesta en lo que pueda pasar después de las elecciones generales que próximamente se celebrarán porque a este gobierno

no le quedan ganas y no le queda voluntad de poner nada a favor de foronda si no todo lo contrario de ir cargándoselo poco a poco que es lo que ha hecho por lo tanto nosotros en la propuesta que ha hecho

nosotros estamos satisfechos en esa parte de mantener viva la llama de esta reclamación y esta reivindicación y supongo que

quizás lo más productivo será volvernos a emplazar para después de unos cuantos meses para después de las elecciones generales y para tratar de abrir una vía de relación con el próximo gobierno de españa que permita que foronda recupere la capacidad la potencialidad y los servicios

derrotistas y agoreros y en clave ya pues electoral

que las cosas se pueden hacer porque hay caminos por los que transitar no mi grupo ha retirado

ya que determinadas circunstancias han superado algunas de las situaciones puntuales y creemos creemos que es mejor moverse en el terreno de los acuerdos

pero yo creo que es un gesto también de nuestra parte el tratar de ver que

que igual haya que poner el punto en algunas otras cuestiones

al acuerdo que el gobierno vasco y que la diputación foral de álava el ayuntamiento de vitoria y la cámara de comercio alavesa suscribieron

sobre el que se puede y se debe articular una posición conjunta una posición de esfuerzo una posición de avance una posición de futuro en relación

además a día de hoy el aeropuerto de foronda está en el buen camino para progresar lo demuestran algunos datos la situación estable que se ha conseguido tras el desarrollo del plan de eficiencia aplicado y acordado

elementos objetivos y que hay que valorar porque eso también es una andadura no ya de pérdidas no ya de retrocesos sino de avance y de poder visualizar un futuro no y desde luego pues la proposición no de ley que mantiene el señor maneiro compartimos

recordar esos avances institucionales de apoyo a foronda sobre una realidad existente

de veinticuatro de noviembre hace pocos meses el gobierno vasco la diputación foral de álava el ayuntamiento de vitoria y la cámara de comercio como referencia y qué se dice vamos a verlo vamos a ver

en qué claves se manifiesta esa posibilidad o esa necesidad de actuación conjunta pues la primera de ellas es que las respectivas representaciones institucionales que ostentan

indispensable para el futuro desarrollo equilibrado de la ciudad de vitoria el territorio de álava

referencia es un planteamiento un objetivo de actuación conjunta de estas instituciones

para impulsar la operatividad inmediata del aeropuerto de foronda para ser

un segundo punto que esa declaración esa manifestación ese acuerdo

entendiendo conjuntamente que su mera implantación supondría un importante avance a tales fines en consecuencia esas administraciones representadas en ese acuerdo sin perjuicio de su particular y legítima visión sobre desarrollo global

impulsar de manera conjunta la implantación de las medidas que luego se dirán y defender la necesidad ante entes y ante administraciones competentes en relación con

con realismo pero buscando la efectividad y en ese sentido el camino no está mal no se desarrolla por malos derroteros viendo algunos de los datos viendo algunas de los anuncios de inversión

pero vamos a ver a qué se compromete el gobierno vasco la diputación foral de álava el ayuntamiento de vitoria la cámara de comercio

fronterizo todas las administraciones firmantes se comprometen a la ejecución de cuantas gestiones se precisen para la cancelación de la suspensión en el menor tiempo posible del puesto de inspección fronteriza sobre la base de las siguientes premisas

que se está haciendo que esperemos que tenga frutos pero es una actuación que se está haciendo vamos a ver que vengan productos perecederos que vengan animales

vigencia inmediatamente pero bueno ahí desde luego se acuerda no proponer la reactivación con independencia orgánica del otro

de la suficiente publicación del nuevo servicio por parte de aena garantizando el mismo

de resultar necesario a la asunción del coste derivado de la reactivación del servicio en términos señalados

material de competencia asume la obligación íntegra de financiación del servicio del pif es decir

los relanzamientos o donde se proyecta la actuación a futuro segunda

del aeropuerto a petición fuera del horario operativo y con la antelación de cuatro horas

suficiente publicación garantía por los medios antes expresados homologación para todos los vuelos que se aplica a solicitudes con una antelación mínima de quince días que se aplica a aeronaves con operaciones charter de carácter estacional operaciones charter puntuales para aeronaves con peso máximo de despegue de dieciocho mil quinientos kilos es decir

con las operaciones con pasajeros las administraciones vascas esas cuatro administraciones las tres

el aeropuerto de foronda por su ubicación y características técnicas tiene una importante oportunidad como aeropuerto de mercado de vuelos de largo radio

requieren de una determinada longitud de pista infraestructuras características es decir

se dan los pasos para que las administraciones actúen conjuntamente ante entes ante empresas ante administraciones es decir se siguen dando esos pasos desde luego que nosotros valoramos más que nada y desde luego además de esos pasos que se quieren dar que se deben dar que se pretenden dar conjuntamente para las operaciones con pasajeros que esperemos pues vayan llegando

pero ahí está pues esperemos que se vaya consolidando y materializando y se vayan

y eso se hace en unión no en desunión eso se hace en unión como en este

del gobierno vasco la diputación de álava y el ayuntamiento del vitoria y también se profundiza en las operaciones de carga y de sector industrial y eso se dice que las administraciones firmantes conscientes del valor del aeropuerto de foronda en carga y mercancías y su potencial

para eso precisamente ahí están las claves identificadas por las instituciones y sobre las que hay que trabajar y seguir valorando

por hacer efectivamente después de los años que se han pasado pero

y eso es lo que tenemos que valorar es decir ya se ha dicho que el plan de eficiencia de aena fue eficaz en foronda en el ejercicio dos mil trece

hubo incremento importante el diecinueve por ciento en el acumulado a diciembre con incremento también del nueve por ciento en movimientos de aeronaves lo cual implica una mayor actividad del aeropuerto es decir en ese sentido

se avanza y se dan los pasos también ha habido noticias importantes porque

para los vuelos de pasajeros fuera del horario operativo o sea que son cuestiones que suponer mejoras avances cualidades con las que foronda se pueda aprovechar y en relación con lo que ya he comentado en el acuerdo pero como efectivo

septiembre del año pasado se hicieron todas las gestiones necesarias con los tres ministerios implicados en la reapertura del pif sanidad agricultura hacienda y administraciones públicas se está a la espera de que las empresas

el servicio o sea presente una carta de intenciones un contrato que justifique la necesidad de reapertura del pif se abrirá y en ese sentido ahí están las necesidades ahí está la cuestión hay que ser realista y hay posibilidades de avance vuelvo a decir la carga

se asientan y noticias importantes que también hay que ver con optimismo es decir

de este mes de abril pasado de este mes abril amplia sus instalaciones en el aeropuerto de foronda

es decir no hay que ser pesimistas no hay que ser agorero

que es el de las instituciones conjuntamente actuando a favor de foronda

de una red aeroportuaria realista objetiva donde se primen

como digo en nuestro grupo político ha sido siempre clara al respecto el objetivo político ha sido

porque estamos convencido de que en la medida en que foronda funcione y le vaya bien como aeropuerto ese beneficio repercutirá sin duda de modo positivo en gasteiz araba y en euskadi ahora bien hay que decir que en el aeropuerto de foronda es una infraestructura de titularidad estatal que gestiona aena

y la competencia es el conjunto de facultades poderes atribuciones y consecuentemente responsabilidades que corresponden a una determinada administración o a un determinado órgano

pero también correlativamente de las responsabilidades que se derivan de la actuación administrativa de ese ente y por tanto de sus responsabilidades políticas por eso hay que decir

dirigidos en la actualidad por el partido popular por eso nos parece que no es de recibo la enmienda del grupo popular exigiendo que el gobierno vasco se implique

no sé si de cinismo pero seguro de escapismo político por intentar eludir sus responsabilidades y evadirse de los problemas que en la actualidad aquejan al aeropuerto de foronda porque como bien se ha dicho si quiere potenciar foronda no tiene más que ponerse a ello señor barrio

de noviembre del año pasado y lo que tiene que hacer como digo es ponerse a trabajar enserio al respecto un acuerdo que tuvo una virtualidad de escasamente quince días porque ustedes se desmarcaron

yo estaba en la creencia hasta ahora de que el partido popular cumplía los acuerdos pero a la vista está que no es así

origen del asunto que nos trae aquí y al respecto decir que

pero tiene un punto de interés el apartado uno

juegan un papel importante en el sistema de transportes de una sociedad moderna y urbanizada como la existente en euskadi intensamente poblada y muy activa económicamente

regiones o países pero debemos decir que la propuesta de upyd nos muestra una cosa y esconde dos a nuestro juicio al menos nos muestra las bondades de la gestión compartida

pero se olvida de dos cuestiones y una de ellas es que esa gestión es posible porque en esos países a los que alude alemania y francia

no como en españa que se gestionan en red de modo centralizado

y la segunda cuestión o el segundo punto que se olvida es que en el estado español hace treinta y cinco años se aprobó una ley orgánica que reconoce la competencia en materia

y nos extraña el olvido de upyd en la exigencia del cumplimiento de la ley que suele ser muy reiterativo en esta

en la que se incluye como digo la transferencia de competencias en materia aeroportuaria

upyd como digo nos propone un modelo de gestión aeroportuario centralizado

un solo órgano que se ubica en madrid decide las inversiones establece las tasas aplicables en cada aeropuerto y la política comercial de los mismos y en este sentido

la asignación de franjas horarias para las operaciones de las aeronaves y para relaciones con las diferentes compañías no se ha realizado ni se quiere realizar una gestión aeroportuaria con criterios que obedezcan a la nueva estructura política del estado ni tampoco

herramienta de control político y de política territorial practicada centralizadamente por el estado el ministerio de fomento y aena concretamente puesto que mediante ese funcionamiento en red que comentaba

y sirve como lo estamos comprobando hoy en foronda para definir el papel que cada aeropuerto juega en el sistema de transporte

como ocurre en la actualidad o recientemente con la actuación del ministerio en los aeropuertos de burgos y zaragoza respecto

pero además de las hache veinticuatro y de la apertura del pif que el aeropuerto de foronda forme parte de los bienes que deben transferirse

para el ejercicio de la competencia aeroportuaria porque la competencia en materia de aeropuertos es una de las transferencias pendientes de materialización como digo treinta y cinco años después de su aprobación

para el bienestar de los ciudadanos y la creación de riqueza económica en euskadi que nos permita distribuirla de manera más adecuada a nuestros intereses hemos suscrito una enmienda muy sencilla y muy clara entre los principales grupos parlamentarios dejando aparte

pero hemos preferido apostar como digo por trabajar

nosotros juntos los que estamos en común y consiste básicamente en demandar del órgano competente

mediante el establecimiento del hache veinticuatro y del puesto de inspección fronteriza y solicitar también el cumplimiento de la ley por eso le solicito particularmente al responsable de upyd que si es respetuoso con el cumplimiento de la ley no tendrá ningún inconveniente en

alcanzado entre euskal herria bildu el grupo socialista y el grupo

de la legalidad vigente y en relación a todo lo que tiene que ver

en el asunto de las transferencias pendientes ya lo he explicado alguna vez pero insistiré en ello bueno algunas cosas no demasiadas

de cada grupo político se decía que es una iniciativa antigua

en repasar qué era lo que decía aquella iniciativa sino que he tratado de plantear este asunto en la actualidad

creo que el tema no lo es y por lo tanto creo que es importante que este parlamento se posicione sobre la cuestión

más allá de que nosotros el segundo punto no lo compartamos porque además no consideramos que sea un asunto relevante

que lo destacable no son las potencialidades de foronda sino la posición del gobierno de españa yo creo que las dos cosas son importantes tanto las potencialidades de foronda como la posición del gobierno de españa es decir yo he querido

una vieja infraestructura porque esté situada en vitoria o en euskadi sino que lo que yo he querido decir es que estamos defendiendo una infraestructura

y que es absolutamente necesaria de impulsar

racional puesto que es el mejor aeropuerto pues evidentemente no tiene sentido la situación en la que se encuentra y por eso defendemos esta infraestructura

infraestructura porque esté en vitoria ni porque esté en euskadi sino que mantenemos una posición racional la defendemos porque es una

hay muy malas infraestructuras que se han creado durante largos años y que sin embargo los distintos partidos políticos las han venido defendiendo por simples intereses

popular lo han repetido todos los portavoces salvo el señor carmelo barrio el responsable principal de la situación en la que se encuentra

es el gobierno de españa es evidente ha habido un boicot absoluto con el propósito de enterrar foronda y sobretodo con el objetivo de beneficiar artificialmente a otros aeropuertos como son los de zaragoza o el de burgos esa ha sido

el gobierno del partido popular tampoco creo yo que el gobierno vasco haya hecho demasiado tampoco creo yo que el gobierno vasco se haya posicionado muy claramente en relación a esta cuestión yo creo que el partido nacionalista vasco y el gobierno vasco podría haber hecho mucho más cuando le interesa en otros asuntos se ha movido mucho más ha presionado más y ha planteado distintas iniciativas cuando ha considerado

no ha hecho demasiado no ha presionado demasiado al gobierno de españa ya digo que la responsabilidad principal es del gobierno de españa del pp pero no creo yo que el gobierno vasco

en fin en relación al señor carmelo barrio yo creo que su discurso no se lo cree ni usted en fin ha tratado de vendernos una especie de lectura positiva pero que está alejada de la realidad yo creo que no se lo cree ni usted dice que usted ha querido fijarse en buenas noticias

ha anunciado una serie de pasos que se pretenden dar en fin son cuestiones que pueden suponer más adelante ya se verá qué

y sobretodo es contrario y contradice todas las actuaciones que se han llevado a cabo durante los últimos meses y durante los últimos años por parte

decía en rueda de prensa que todas las gestiones están realizadas y que la resolución de esta cuestión es cuestión de pocas semanas y el señor maroto

tan genuina de febrero de dos mil catorce decía aquello de

un acuerdo entre el partido popular el partido socialista y el partido nacionalista vasco en madrid sobre el aeropuerto de foronda en fin palabras que se las ha llevado el viento necesitamos hechos no palabras y es evidente cuál es la posición política del partiendo popular no le interesa foronda prefiere beneficiar

por simples intereses electorales partidistas o políticos y en relación

yo estaría dispuesto a votar a favor del primer punto porque evidentemente recoge algo que defendemos todos salvo el señor carmelo barrio

defendemos el cumplimiento de la ley pero lo que son las transferencias pendientes del estatuto de gernika no es algo que pueda producirse de manera

no se produce de manera automática ese cumplimiento de la ley y además upyd puede optar si lo considera que es bueno para la sociedad que determinadas transferencias no

decidir no instar a ningún gobierno a que negocie ninguna transferencia porque consideramos que en este caso concreto o en otros muchos

de la sociedad respeto al cumplimiento de la ley por supuesto respeto a que ustedes pidan al gobierno de españa negociar sobre esta transferencia u otra también

es exigir las transferencias solo aquellas que sean necesarias y no

gracias señora presidenta señor maneiro yo decía al principio que coincidía con muchas de las afirmaciones que el espíritu inicial de la proposición no de ley que usted planteaba

lo creo además porque son hechos objetivos es decir yo le he hablado de un acuerdo interinstitucional

negro sobre blanco ahí las tiene y todas hablan de lo que hablamos todos

y de su desarrollo y de buscar sinergias y actuación conjuntas

trato desde esta cámara como parlamentario de impulsar a otras instituciones para buscar

algunos sí que se encuentran cómodos en el discurso derrotista agorero

quieren no lo digo por usted señor maneiro efectivamente que foronda vaya mal

nunca partido nacionalista vasco y sus gobiernos nunca

nada partido socialista tampoco nunca jamás o sea el partido nacionalista fue incapaz cuando negociaba los presupuestos de zapatero

destruyó aena la quebró luego lógicamente ha tenido que recuperarse pero esas son las cuestiones de verdad efectivamente

efectivamente cuando una nefasta gestión de aena y a un gobierno y tiene que

y el desaguisado pues va y lo hace y efectivamente a veces es complicado pero ahí está un plan de eficiencia en foronda

tiene un plan de marketing y todos lo conocen en relación con foronda

algo que quiere cerrar o que quiere acabar no al revés quiere buscar sinergias impulsos efectivamente

podemos instar al gobierno de españa a que haga más cosas y lo hacemos

alavesas en ese sentido el recurso fácil es arremeter contra el partido popular pero

de trabajar de buscar acuerdos como el que yo he puesto en valor antes y de que ustedes también lo respalden esos acuerdos no los critiquen ya de raíz sino que se busquen ellos la semilla de lo que es seguir trabajando y seguir avanzando yo creo que esa es la cuestión no es decir efectivamente los presupuestos

el gobierno vasco mucho más se puede implicar mucho más su departamento de promoción económica sus capacidades

y nunca lo ha hecho señor aldaiturriaga desde el gobierno la última vez por la presión

ustedes prefirieron meter dinero a epsilon e hiriko

no es muy estilo yo no soy partidario de entrar a discutir con los grupos políticos que hemos suscrito una enmienda

cuestiones que no aparecen en el mismo y sobre determinados comportamientos políticos y en este sentido quiero responder tanto al grupo upyd aunque evidentemente no es el caso porque no ha firmado la enmienda pero sí de euskal herria bildu diciendo que el

eso no es ni aproximado a la realidad el partido nacionalista vasco ahí donde ha podido siempre ha trabajado por la potenciación del aeropuerto de foronda y bueno decirle que en el último año lo primero que hay que hacer y esto vale también para el partido popular es que es una decisión que

de adoptarla el titular de la misma tanto de la infraestructura como de la gestión y en este caso coincide que es la administración del estado a través del ministerio de fomento y de aena por eso precisamente solicitamos la transferencia de la gestión de los aeropuertos

podremos adoptar decisiones y se podrá responder políticamente podrá responder políticamente el gobierno vasco sobre este asunto pero les decía que

ha presentado tres iniciativas que han sido sistemáticamente rechazadas la última

en el que se pedía la creación de una partida por importe de siete millónes de euros para el reestablecimiento del hache veinticuatro una enmienda que bueno pues ha sido

yo creo que es absolutamente injusto achacar al partido nacionalista vasco que no se implique en este asunto y

básicamente decir

es en el congreso y en el senado donde el grupo popular plantea boicotea este tipo de iniciativas

buenos días señorías buenos días lehendakari no parece no parece

sobre todo el derecho a morir dignamente forma parte de la agenda de asuntos a resolver por eso hoy hemos venido a hablar de esto

más íntima y los socialistas señorías siempre hemos creído en la libertad de cada persona con independencia

este no es un debate fácil es un debate complicado lo sabemos pero no más complicado que el resto de todos los debates sociales que hemos conocido

relativos a las decisiones individuales personales íntimas que empezaron despenalizándose y acabaron garantizándose como derechos

hablo de la libertad sobre la opción sexual de cada cual decisiones

han pasado a formar parte del catálogo de derechos y libertades de las sociedades decentes nosotros hoy queremos abrir

hacia la libertad de decidir sobre la propia muerte

pueda conllevar un castigo cuando para el ejercicio para la ejecución de esa decisión sea necesaria la cooperación de un tercero nuestra iniciativa parte de una constatación estamos tramitando en este parlamento una proposición de ley de bildu

y lo estamos tramitando porque todos los grupos votamos a favor de hacerlo esta ley como saben pretende establecer una regulación específica sobre derechos de las personas

en otras comunidades como por ejemplo andalucía o navarra pero desde nuestro punto de vista no aborda el núcleo central de este asunto no aborda

que no es otra cosa que la posibilidad del ejercicio del derecho individual de cada persona de determinar todas las circunstancias que deben concurrir

para conseguir su disponibilidad sobre su vida y sobre su propia y también señorías cuando una persona cuando esa persona puede tener un impedimento de cualquier tipo para ejecutar de manera autónoma la decisión de terminar con un sufrimiento psíquico o físico irreparable pero además señorías que si llegamos a consensuar en este parlamento espero que sí un texto normativo que sí lo haga que sí aborde lo que nos parece necesario para garantizar la disponibilidad de las personas sobre la propia vida esa expresión existencial

tendríamos un obstáculo insalvable que no es otro que el artículo ciento cuarenta y tres del código penal con claridad meridiana

el código penal que como saben ustedes es una ley orgánica y sin esa modificación no podremos garantizar el que alguien pueda colaborar

para poner fin a ese sufrimiento en el ejercicio de esa decisión y propia y personal del afectado esta reflexión

en este parlamento y la hemos escuchado a muchos a muchos

y nosotros hemos impulsado esta proposición no de ley con esa orientación que el parlamento vasco inste al gobierno de españa para que se quite la venda de los ojos

y dé los primeros pasos para abordar de una forma abierta clara sin eufemismos la necesidad de garantizar ese último acto de ejercicio de la libertad individual y lo hemos hecho señorías

con aquella llamada constitución negativa con el código civil de la democracia que impulsamos los

seguridad jurídica en la toma de decisiones libres de los ciudadanos en la gestión de sus personales situaciones de sufrimiento aquella reforma del código penal de mil novecientos noventa y cinco ya dio seguridad jurídica

a las prácticas clínicas mitigadoras del padecimiento que se estaba llevando a cabo con los enfermos terminales y sobre los que algunos entonces y ahora

sanitarios de aquello han pasado veinte años y creemos que este es el momento creemos que debemos abrir este debate en su totalidad y completar lo que se quedó sin regular en el año mil novecientos noventa y cinco

la iniciativa que hoy debatimos éramos conscientes de todas las dificultades

una receptividad mayoritaria de este parlamento a nuestra reflexión y aunque pueda parecer que hoy nos quedamos cortos que lo que hoy aprobamos sea una mera declaración de intenciones no nos parece un asunto menor abordamos sin tapujos

lo que queremos abordar pero que no podemos resolver desde nuestras propias competencias fijamos posición común compartimos la necesidad de reformar las leyes para hacer posible ese último acto de ejercicio

cuando no se puede ejercer de forma autónoma el debate señorías está en la sociedad desde hace tiempo

de la actuación política el derecho

pero yo creo que no nos equivocamos cuando afirmamos que existe una demanda social y un consenso ético a favor del reconocimiento de la disponibilidad sobre la propia vida la política señorías está obligada a atender

el latido del corazón de la ciudadanía y eso es prueba y síntoma evidente de la buena salud de las instituciones democráticas creemos

creemos que debemos abordarlo y creemos que podemos llegar a un buen consenso es así más allá de la aportación limitada que nosotros hagamos desde este parlamento

todos los grupos parlamentarios de esta cámara se mostraron favorables a tramitar la ley aquí y nosotros esperamos

esta cuestión en su integridad de momento digamos alto y claro que este parlamento no quiere que nadie sea castigado porque se garantice a cualquier persona el ejercicio último de libertad de su vida

a los grupos enmendantes su disposición para el acuerdo y cómo no solicito de los no enmendantes su apoyo

a fin de despenalizar el tipo recogido en el artículo ciento cuarenta y tres del código penal sin frivolidades consensos siendo muy conscientes de cual es la realidad que la sociedad nos demanda somos conscientes de que diferentes

con el consiguiente envejecimiento de la población y aumento de las enfermedades crónicas e irreversibles también ha cambiado el tipo de atención sanitaria

caracterizado por un total protagonismo del profesional sanitario paulatinamente se ha ido abriendo paso a un modelo de responsabilidad compartida en el que la persona enferma participa cada vez mas de la toma decisiones de su proceso de curación tratamiento

estamos asistiendo a una mayor toma de conciencia y consideración de las necesidades de las personas en situación

de toda persona de edad muy avanzada o de aquella a la que se ha diagnosticado con certeza un padecimiento avanzado incurable progresivo que no responde a tratamientos específicos

y también de las necesidades de quienes padecen enfermedades incurables degenerativas

invalidantes todo este conjunto de antecedentes y circunstancias constituyen una buena oportunidad para reflexionar sobre cuáles son las dimensiones éticas de la idea de muerte digna qué derechos tienen las

y cuáles son las obligaciones de las administraciones publicas y del sistema sanitario para con ellos así como para aportar la mayor seguridad jurídica

tanto en la vida diaria como en la práctica sanitaria eta guzti hau aurrera eraman ahal izateko kode penala aldatzea beharrezkoa da esan dugun moduan

justificación del grupo socialista para presentar esta iniciativa es que en alguna comparecencia de las que se han producido con motivo de la proposición de ley de eh bildu

no servirá de nada lo que se haga en este parlamento por eso se propone a través de esta iniciativa la modificación del código penal y a nosotros nos parece bien nos parece bien la propuesta y nos parece bien la modificación del código penal para despenalizar el suicidio asistido y por lo tanto votaré a favor

con la propuesta original que también nos parecía bien es cierto como se ha dicho que antes el grupo socialista o el partido socialista no lo propuso cuando pudo pero en fin

y nosotros lo celebramos la resolución ciento noventa y siete del segundo congreso de upyd de noviembre de dos mil trece dice lo siguiente proponemos avanzar en la regulación legal del derecho a la muerte digna es decir

o eutanasia en situaciones donde la persona interesada plenamente consciente e informada no puede decidir y actuar por sí misma a consecuencia de cualquier impedimento físico

a un sufrimiento insoportable la regulación de este derecho deberá tener en cuenta la máxima protección jurídica del solicitante y del profesional dispuesto a auxiliarle

y reiterada con plena información y coincidencia del afectado y del personal sanitario eso es lo que upyd apoya por lo tanto upyd está claramente a favor de lo que se propone en esta iniciativa y un servidor personalmente

se propone yo lo resumiría en una frase que está recogida en la sentencia del tribunal supremo canadiense que legalizó el suicidio asistido el derecho a la vida no debe transformarse en obligación de vivir y en otra frase que es una especie de máxima de los grupos

en los procesos finales de la vida dormir antes de morir para no sufrir

que igual está más pillada por los pelos pero que a mí me gusta mucho la cuestión no es si hay vida después de la muerte sino que haya vida antes en definitiva por estas

han expresado perfectamente en sus largas intervenciones votaré a favor de la transaccional eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza

señora gallastegui usted es una buena compañera yo creo que es una buena amiga

buena jurista es una hábil parlamentaria pero debe de tener alguna dificultad en residenciar este debate donde corresponde

no le hace caso su grupo parlamentario en el congreso o

con que hay que reformar urgentemente el código penal o no sé todos los demás además tienen grupo parlamentario

el partido nacionalista vasco bildu

reformar el código penal materia típica de las de libro

de una cámara parlamentaria reforma del artículo

potentes con capacidad de presentar iniciativas y de que se sustancien y de que se tramite

nosotros estamos estudiando una proposición de ley sobre el proceso final de la vida en este parlamento

ese debate nosotros vamos a centrarnos en trabajar en ese ámbito de actuación parlamentario en relación con una materia que podemos regular vamos a trabajarlo y

que enfocar lógicamente yo no voy a entrar creo que no se ha hecho en el fondo de la cuestión ha entrado de una manera más detallada pero en el fondo de lo que

entiendo que no es mejor donde corresponde este debate no es mejor que ustedes lo promuevan

con un debate además que muchos han hablado un debate responsable

científico médico ustedes

definir legalmente a golpe de voluntarismo parlamentario yo creo que no

debate parlamentario tramitación parlamentaria reforma legislativa además es un poco distorsionador mezclar

de ley no sé estamos en periodo de enmiendas prácticamente bueno todavía quedan algunas comparecencias si mal no recuerdo estamos estudiándolo ya y usted propone un debate una

muchos meses años igual igual la quiere instalar pero en ese sentido

nos hemos centrado nos podemos centrar en la proposición de ley que estamos estudiando nosotros hemos admitido a trámite no la considerábamos necesaria pero

que se planteaban ya estaban reguladas de una u otra manera por nuestra normativa de salud sanitaria

que podíamos entender que estaba regulado pero bueno

pensar que todos podemos pedir que cualquier cámara en cualquier cámara que se modifique la legalidad de que dependa de otra pero no se puede hacer mejor in situ

si sus propios compañeros cuando han abordado este tipo de debates en el congreso de los diputados han hablado de debate sosegado debate tranquilo de que hay que profundizar

hace unos años unos cuantos en dos mil ocho se comenzó una campaña

quién gobernaba entonces el partido socialista qué hizo nada dos mil nueve pues una iniciativa en el congreso en relación con esta cuestión y el psoe

también a la despenalización de la eutanasia dos mil doce se reproducen los debates y psoe también se opone a la consideración de estas iniciativas ahí está la clave ahí está

donde corresponde ahí donde además va a tener efectividad ese cambio

llévenla por favor al congreso o al senado profundice todavía en esas claves de reforma de la ley de una ley

se han referido que es el código penal donde ahí se puede modificar si se
consiguen las mayorías suficientes muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

bien señora ubera usted me hablaba de por qué habíamos interpuesto esta iniciativa legislativa de carácter menor y venía a decir que

una consistencia desde el punto de vista parlamentario bueno yo tengo que disentir

de esta iniciativa es que tenemos el problema tenemos el obstáculo insalvable de un artículo de una ley orgánica

que es en este caso el código penal que nos va impedir

cualquier ley que consigamos consensuar en este parlamento en relación con la muerte digna y con la eutanasia y sí nosotros hacemos una ley estupenda

que solucione la disponibilidad de las personas a decidir cómo quieren morir pero resulta que todos y cada uno de aquellos que ejerzamos ese derecho

tenemos un problema muy serio y nosotros no tenemos competencias como ya sabemos por lo tanto parece razonable

como en tantas otras ocasiones señor barrio porque esto es prerrogativa de los parlamentos pueden instar al gobierno de españa tendrán la capacidad

pero pueden instar y de hecho lo instan planteaba usted señora ubera también

de totalidad a la proposición inicial eso de en fin que tomáramos una iniciativa legislativa impulsando esta reforma ante las cortes españolas no nos parece una mala opción pero usted y yo ya hemos hablado de este asunto pero sabe perfectamente igual que yo

tal y como está la legislatura actual no nos iba a permitir hacer una tramitación lo que sí le digo y le digo al resto de los grupos de esta cámara que por cierto todos tienen representación en cortes generales o en sede de congreso en sede de senado que cuando la próxima legislatura que nosotros estaremos gobernando tenderemos la mano

para que cumplan lo que ahora están diciendo que quieren cumplir y en ese sentido desde luego el planteamiento va a ser

tejer complicidades forjar acuerdos sobre todo para garantizar al final lo que venimos a pedir aquí

quiera morir tenga que morir lo haga con dignidad

de ese momento existencial de una manera absoluta me decía

el señor barrio que hay que hacer las cosas donde se corresponde efectivamente y allí también lo haremos

y lo hemos venido haciendo y de hecho es muy probable es muy probable que en breve se vuelva a presentar además que ya en la próxima legislatura probablemente como le digo

para tender esa mano que en cuatro años no ha existido por ninguna parte porque en definitiva

suplido la inacción la inacción del gobierno a la hora de buscar y de hacer propuestas

representación en el congreso podían haber iniciado conversaciones para modificar el artículo ciento cuarenta y tres del código penal en sede de congreso español

tienen ustedes representación y de hecho eso

de lo que se trata fundamentalmente señorías es de poner en valor

y en la medida de la capacidad que tengamos de exigir del gobierno de españa que se ponga las pilas para

la vida de los ciudadanos cómo establece iniciativas normativas legislativas que vayan a mejorar la vida de los ciudadanos y no que siga haciendo lo que ha hecho hasta ahora que

absoluto oposición por parte del resto de los grupos parlamentarios cuando pase eso nosotros como digo reitero estaremos esperándoles esperándoles con las manos abiertas con las libretas abiertas para ver cómo gestionamos todo eso

y también le emplazo a todos a que con independencia de lo que pase después tenemos delante una ley que podemos darle una vuelta muy importante muy importante y superar de manera reitero importante la vida la mejora de la vida
de todas las personas que es en definitiva para lo que estamos aquí eskerrik asko gallastegui andrea

labur labur señor barrio somos conscientes que es una cuestión que

pero se ha planteado una proposición no de ley por parte de un grupo y nosotros no hemos hecho más que posicionarnos dando lugar a una transaccional que en breves se aprobará sí que dejando de lado el debate competencial a nosotros en nuestro grupo nos gustaría apelar a la responsabilidad

que es nuestra obligación aportar la mayor seguridad jurídica a pacientes familiares y profesionales a la hora de aplicar sus contenidos tanto en la vida diaria

y en la práctica sanitaria y en ellos estamos trabajando desde el máximo de los respetos y el rigor nada más

el valor de las leyes y de sus reformas en relación con la tramitación de estas proposiciones no de ley o el uso de las mismas para eso es decir vamos a ver vamos a centrarnos en nuestra proposición de ley tenemos en la cámara o sino que se retire a la espera de la reforma del código penal porque sino estamos teniendo una sensación de que vamos a realizar una reforma estéril una reforma sin ganas y eso muchas veces es lo peor el espíritu de las leyes

si lo hacemos de esta manera yo creo que en ese sentido por eso como estamos hablando de una cuestión de tiempos

a la señora gallastegui a que convenza a su grupo parlamentario en el congreso y en el senado

y con el apoyo de los demás en esa andadura de reforma es decir

el congreso de los diputados ha rechazado la regulación de la eutanasia con el voto en contra del partido popular y el partido socialista a una iniciativa de la izquierda popular para impulsar una ley orgánica sobre disponibilidad de la propia vida es decir

habla de la posición de la información

similares se refirió el diputado socialista julio villarrubia quien recordó no obstante como el anterior tal defender

sin dolor y con el pleno derecho a la voluntad de las personas pero sin hablar de eutanasia es que

claro hay que aclararse y como se tiene que aclarar el partido socialista en esta materia que se aclare donde lo ha confundido donde está confundido

al objeto de la reforma legislativa muchas gracias eskerrik asko barrio jauna eztabaida amaitu denez